muchas gracias presidenta la iniciativa

que instemos a los ayuntamientos de gipuzkoa a paralizar de forma inmediata la implantación del sistema puerta a puerta y que instemos a la diputación foral de gipuzkoa a impulsar

nueva transaccional muchas más completa que ha surgido

y que lógicamente se parece bastante a la que ya se aprobó en este mismo parlamento

hace un año se planteaba inicialmente incluso

de enmienda transaccional pedir a los ayuntamientos guipuzcoanos que paralicen la imposición del sistema puerta a puerta y nosotros lógicamente

instamos a los ayuntamientos guipuzcoanos a paralizar la imposición

puerta a puerta en fin no tenemos ningún tipo de problema en ello aunque también habría que reconocer que en algunos ayuntamientos ciertamente aunque no nos guste hay una mayoría de ciudadanos que están dispuestos a seguir defendiendo este sistema que nosotros en todo caso

estamos de acuerdo en pedir su paralización en aquellos municipios que hayan mostrado un rechazo mayoritario

que cuente con el respaldo mayoritario de los ciudadanos podemos hacerlo al fin y al cabo nosotros representamos al conjunto de los ciudadanos vascos

podemos hacerlo es legítimo hacerlo esté o no en este parlamento las competencias

representamos al conjunto de los ciudadanos en nuestra opinión es un disparate es un exceso

tratar de impulsar especialmente determinadas actuaciones como el sistema puerta a puerta de espaldas o en contra de una gran parte de la población es decir imponerlo eso crea disenso y enfrentamiento como estamos viendo

la convivencia como ha ocurrido en diversos pueblos de gipuzkoa cuando además

de estas características necesita del respaldo activo y el compromiso de la ciudadanía lo cierto es que eh bildu ha dado la espalda a todo esto y se ha encontrado con la reacción de los ciudadanos en los diferentes pueblos de gipuzkoa

con la finalidad de incrementar los umbrales de reciclaje de residuos urbanos y somos favorables a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para avanzar en la vía de la valorización de los residuos para llevar nuestras tasas de reciclaje al nivel de los países más avanzados impulsando la colaboración ciudadana la cual es absolutamente indispensable y teniendo en cuenta el respeto debido a la misma lo cual es obviamente

eh bildu no hace y obviamente apoyamos la reducción de la generación de residuos el aumento de la reutilización

el fomento de la información y la formación acerca de las diferentes fracciones el fomento del autocompostaje las campañas sobre la necesidad de consumir productos reciclados y el consumo de compostaje destinado a regenerar

la mayoría de este parlamento respecto al plan integral de gestión de residuos urbanos de gipuzkoa pensamos nosotros desde upyd que este plan debería ser

no hemos firmado esa enmienda de transacción en nuestra opinión se fundamenta en un objetivo crear una gran incineradora

pues ahora la cantidad de residuos que se espera recibir es mucho menor y además condiciona el aumento del nivel del reciclaje al necesitar un mínimo de residuos reciclajes para funcionar en nuestra opinión y ya se ha dicho por parte de los diferentes portavoces eh bildu está imponiendo de forma un sistema de recogida muy conflictivo sin consenso político y sin informar debidamente ni consultar a los ciudadanos sin plantearse otras alternativas obviando la situación real de gipuzkoa sin atender ni estudiar la situación

décadas de ventaja ante esto nosotros

llamamiento al sentido común al consenso y a respetar

en los últimos tiempos en gipuzkoa nunca lo ha hecho y en este asunto en concreto sigue sin hacerlo nosotros abogamos por reciclar y compostar la mayor cantidad de residuos posible usando los distintos sistemas de recogida basados en la separación en origen que pueden ser complementarios entre sí

como último recurso y contemplamos y defendemos también la actualización

acometerse y no se ha acometido en los últimos tiempos y parece que no hay decisión mayoritaria por parte de los partidos políticos de actualizar este plan frente a la incineradora negocio proponemos una incineradora

para los residuos que no se puedan reciclar y buscando siempre el objetivo de basura cero en fin esta es la posición de upyd en este debate

que también no solo para denunciar sus modos y maneras que también no solo para denunciar sus imposiciones que también esperamos y lo digo muy sinceramente que este debate sirva también para buscar una solución al problema de la recogida de basuras

en gipuzkoa en fin esperamos que sirva para eso pensamos que hay mucho margen para aprender y mejorar más allá de las luchas partidarias gracias

gabinete buru izatetik diputatu izatera hau da tanto monta monta tanto eta

bilduren politikaren aldeko izatea hace un año justo hace un año

bildu presentó algo y nunca más se supo del algo que presentó

de memoria ese fue el nombre con la intención de que colara cosa realmente difícil rayana en lo imposible que no era un plan que requiriera de la aprobación de las juntas generales sino que simplemente lo que pretendía era adaptar el plan vigente hoy en día cuando en realidad

a su contenido y el plan lo que proponía era los famosos depósitos de balas de residuos energizados que es un

vertederos de basura empaquetada en cantidades industriales de plástico solo sabemos que hoy tenemos tres vertederos en gipuzkoa sasieta lapatx y urteta y están los tres al borde del colapso y no

siempre hasta que se construyera la planta incineradora

de cuándo se vaya a cumplir la condición que vaya a finalizar con esa situación en el gara hace un año titulaban a doble página

pues dos mil catorce está a la vuelta de la esquina y nadie sabe nada y da la impresión de que la propia diputación sabe como todos los demás no existe alternativa y qué más ha hecho bildu manipulado la información por decirlo de una manera suave

muy brevemente porque para responder a tantas cosas de las que acabo de tener oportunidad de escuchar ni cinco

ver las piruetas los ejercicios de funambulismo que algunos tienen que hacer para justificar cosas verdaderamente difíciles de justificar es verdaderamente entrañable ver aquí

de eh bildu hablando de ámbitos competenciales del respeto a los ámbitos competenciales

es verdaderamente curioso ver a alguien de bildu en esta

hablando de la necesidad de hacer modificaciones legales y no meternos donde no nos corresponde en las competencias de otros es curioso y eso solo se puede entender cuando uno trasciende de la pancarta a la gestión cuando los discursos que sostiene la pancarta una vez que hay que pisar

no solo gritarlos sino solucionarlos es cuando generan estas

la que hemos tenido oportunidad de asistir ahora porque el problema no solo es de pinchos y de cubos

solo de pinchos y de cubos que también por que tenemos derecho los ciudadanos a no querer que no

indecentes también es un problema pero no solo es un problema de la alternativa que ustedes ofrecen a algo que estaba aprobado y acordado

y es como si el mundo se hubiera puesto el contador a cero y no es así había un trabajo tremendo de fondo

sobre el tratamiento de las basuras en guipúzcoa no solo su recogida que también

y ustedes llegaron y lo desecharon sin ningún tipo de acuerdo sin ningún tipo de entendimiento con nadie unilateralmente lo desecharon y el problema añadido al de los pinchos y los cubos

nada cero y hoy no existe una alternativa

para saber qué va a pasar con nuestras basuras cuando por ejemplo los vertederos se colmaten o cuando por ejemplo tengamos que hacer efectiva las directrices de la unión europea que le impiden y prohíben la existencia de vertederos y esa alternativa no existe y es un problemón

desagradable de los pinchos o de los postes y de los cubos tenemos un problema de gestión real gravísimo al que ustedes y solo ustedes nos han condenado

de pinchos y de cubos o de cómo gestionarlo es un problema

que bildu está ejerciendo y lo podrán vestir como quieran lo podrán argumentar de la manera que más les interese pero durante treinta y tantos años hemos tenido que estar soportando el mensaje de que no se hacía caso a la voluntad del pueblo y cuando ustedes tienen la oportunidad de predicar con el ejemplo

y no nos venga con que habrá que cambiar el sistema de elección cuando podamos

ustedes tienen la oportunidad de demostrar eso que tantos años llevan predicando y a la mínima oportunidad no lo hacen y es que no es que sea dubitativo es que pueblos donde ustedes tienen una representación importantísima donde gobiernan con mayoría absoluta la mayoría del pueblo les dice que no quieren aquello que les están imponiendo y usted aquí nos viene a decir que hay que ser pedagógicos que la gente ya entenderá que hay que convencer

la realidad es triple y esto es una cochinada en cuanto al sistema de recogida

es un problema de gestión porque no hay alternativa porque el problema de la recogida pero luego es qué hacemos con esa basura es un problema de imposición de su manera de entender la gestión política

y es conmigo o contra mí y en cualquier caso lo que yo quiera

estamos debatiendo aquí defender a los ciudadanos que no están dispuestos a aceptar esa imposición no es señor maneiro no pretendíamos traer aquí una reflexión sobre la forma el tratamiento de las basuras

acordado y respaldado técnicamente estamos hablando de cómo se pisotea la voluntad de los ciudadanos una vez más ahora en temas de gestión pisotea la voluntad mayoritaria del pueblo y eso es lo que afortunadamente hoy vamos a ser capaces de rechazar con la mayoría

muchas gracias señora presidenta miren yo creo que en política

es muy importante es la coherencia señora beitialarrangoitia

ustedes hoy en esta tribuna quieren dar lecciones al señor vicente reyes

qué es más que un capricho para bildu la implantación del puerta a puerta

la indemnización de la incineradora a través de las tarifas de la basura ustedes hablan y son los defensores de la participación ciudadana pero la participación ciudadana cuando a ustedes les interesa cuando a ustedes les interesa porque ha habido un referéndum

y el alcalde de su partido sigue insistiendo

parte del puerta a puerta parte quinto contenedor pero tiene razón yo le voy a dar una razón el ayuntamiento tiene legitimidad

qué sistema puede implantar pero implantarlo en contra de la voluntad de los ciudadanos eso se llama imposición lo miren como lo miren por arriba por abajo por un lado o de otro pero es una imposición

es muy recurrente lo que ustedes hacen confundir debates porque un debate es el sistema de recogida de residuos y otro debate es el sistema de tratamiento de dichos residuos

que la solución para no construir la incineradora es la implantación del puerta a puerta cuando no es verdad qué hacemos con la fracción resto

desgraciadamente tiene que ir en la incineración por lo tanto y sí es verdad

lo indecible todo lo que podía recurrir porque los ciudadanos de mi pueblo no lo querían pese

partidario de la incineración pero yo hice lo que mi pueblo quería

un sistema como el quinto contenedor o el puerta a puerta aquí

una planta de compostaje en guipúzcoa que es lapatx que está absorbiendo

con el orgánico qué hacemos es que la diputación foral de guipúzcoa tiene que dar una salida

qué sabemos de ella es que qué sabemos de ella ustedes ya han dejado bien claro que bildu no quiere la incineradora bueno no todos los de bildu porque dentro de sus filas

que en el departamento de medioambiente elaboró un plan director para euskadi en el cual no solo establecía una incineradora sino dos

la miran bien o la tienen de lado dentro de su formación política no sé ya la portavoz del partido nacionalista vasco ha dicho que la alternativa que ustedes plantean

algo que incumple la actual normativa europea de residuos que es la de verter

pero dónde es que no dicen ustedes dicen en las canteras guipuzcoanas

en cuál de ellas vamos a quitar aquellas que sean pequeñas

acceso nos quedamos con veinte que son zegama

en andoain en bergara en urretxu en legorreta

dónde quiere plantar estos vertederos la diputación foral de es que no lo dice y los guipuzcoanos tienen que saberlo además usted ha hecho comentario de que el puerta a puerta es el sistema de recogida de residuos que mejor resultado da

eso es mentira porque ustedes falsean la información y ya que me han nombrado

y ustedes niegan que existe un turismo de basura en guipúzcoa

pero yo tuve que pagar las consecuencias de su implantación de su imposición porque simplemente y se puede demostrar con hechos es coger las facturas

y verá que desde la implantación del sistema del puerta a puerta en hernani el ayuntamiento de lasarte oria ha tenido que pagar más a esa mancomunidad

más guarros hemos producido más residuos no porque estamos pagando lo de hernani

pero también por qué no dicen que desde la imposición en hernani del sistema del puerta a puerta se han incrementado

en la vía pública por parte de los barrenderos por qué no dicen

ustedes miran para otro lado y dicen no es que se recicla más de un ochenta por ciento cuando es mentira la basura no desaparece

viene a lasarte oria muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

egiteko beharrezkoak direnak banco europeo de inversiones banku publikoa eta

aipamena producto especulativo financiero claro

la típica cuestión que parece que cala fácil pues ni especulativo ni nada un seguro de cobertura

que afrontar el posible riesgo a los veinte años del crédito de la vida del crédito del incremento de los tipos de interés que ya sabemos que en este momento qué casualidad

dios dirá si es que ese crédito existe y lo de la especulación es algo que le añade la inacción de bildu porque a cuanto menos aplicar el crédito obtenido a las inversiones a realizar más diferencia entre eso que no se ha ejecutado y el gasto que hay que pagar

pero si fuéramos a eso y lo comparáramos con los créditos que ha conseguido el ayuntamiento de donostia o el ayuntamiento de oiartzun últimamente uno de seiscientos mil euros y el de donostia no sé si eran diez millónes y medio esos sí que son

que el de ghk para financiar las infraestructuras de residuos hipocresía el colmo de la hipocresía errausketa omen da kaltegarria

el parlamento vasco hace un llamamiento a las instituciones públicas

para que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida